consejera consejero conozco a la señora garrido y seguro que la respuesta es no la interpelación que presento en nombre del grupo popular hace referencia nuevamente a un tema antiguo nuevamente hablamos de un antiguo compromiso de gobierno liderado por el pnv incumplido

van unos cuantos hablamos del abastecimiento del valle de zuia y ayuntamiento de urkabustaiz

el paso del tiempo ha agravado la situación principalmente por el aumento de población en los últimos años estimada está en un treinta por ciento

esta carencia es especialmente visible los meses de verano con una demanda exponencialmente superior al resto del año hablamos de los meses de junio julio agosto y septiembre

ocasionando graves problemas a los vecinos para el abastecimiento diario de los usos habituales de una residencia normal

necesarias para solucionar el déficit de agua para abastecimiento del valle de zuia

en junio de dos mil seis el ayuntamiento de zuia aprueba en pleno por unanimidad

presentado por el gobierno vasco para el abastecimiento de zuia con este texto la corporación municipal acuerda por unanimidad ratificar dicho anteproyecto solicitar a la dirección de aguas del gobierno vasco la máxima urgencia en la tramitación del citado proyecto ante la situación de alerta que sufre el municipio de zuia en el servicio de abastecimiento en la época estival

además de este compromiso de este acuerdo municipal se dicta un boletín municipal para los vecinos donde en portada se dice

y la solución proyectada es la construcción de una infraestructura de abastecimiento para garantizar al menos una dotación

y de cinco coma ocho litros segundo para urkabustaiz se construirá una balsa reguladora de cuatro

de sarria año dos mil seis como se puede apreciar la maquinaria electoral por delante

y forales y además el alcalde de zuia

al grupo de ea y la consejería también estaba liderada

y medio ambiente de la diputación foral de álava decide suspender la aprobación definitiva de la revisión de las normas subsidiarias de planeamiento de zuia en tanto en cuanto no se subsane la deficiencia consistente en garantizar el suministro de agua necesaria

del modelo territorial propuesto en las nuevas normas

también les dice que la subsanación de esta deficiencia posee

su cumplimiento requieren una nueva exposición pública y volver a remitir a diputación para su aprobación definitiva

la señora viceconsejera de medio ambiente y ordenación del territorio o sea usted misma señora consejera firma un documento que envía a la diputada de urbanismo de la diputación foral de álava que lo tengo aquí tengo aquí una copia de su documento donde dice

habla del proyecto habla del calendario habla del presupuesto trescientos ochenta y siete mil euros presupuesto del año dos mil siete setenta y siete mil dos mil ocho que

que estarán en condición de licitar las obras de construcción en febrero de dos mil ocho por lo cual ya hemos realizado las reservas presupuestarias necesarias

que hagan posible el suministro de agua que se necesita para el modelo territorial propuesto en el documento de revisión de las normas

terminada para dos mil diez y estará en condiciones de suministrar agua a las

en las nuevas normas subsidiarias ante estos datos cualquiera de ustedes pensará que a día de hoy octubre de dos mil catorce

después de tanto bombo después de tanto platillo el gobierno se olvidó y la realidad es que si en dos mil seis el ayuntamiento de zuia hablaba

hoy se sienten engañados y desamparados porque el gobierno no inició la obra en el dos mil ocho tampoco en el dos mil nueve llegó el gobierno socialista y dijo que se iba a finalizar para el dos mil doce

y llegó este gobierno como consejera la misma que se comprometía por escrito para iniciar las obras en el dos mil ocho lleva dos años y nada sabemos de todo aquello seguro que ahora nuevamente coincidiendo con las elecciones

hará usted algún movimiento o no porque como no coincide con la alcaldía de zuia en cuanto a política pues probablemente igual no interesa

en dos mil siete por qué no se iniciaron las obras en el dos mil ocho como dice esa carta por qué llevan casi dos años de gobierno nada para retomar este asunto y ejecutar la obra que tan necesaria es

en la cuenca alta del río y una presa reguladora en un punto próximo a los municipios abastecidos y localizados en el arroyo de zarro fuera del cauce principal del río baias

y la conducción de abastecimiento de alta este proyecto está terminado se licitó en aquella época y se terminó pero lo que no nos ha dicho usted señora lópez de ocariz y

es que la ley treinta barra dos mil cinco de veintinueve de diciembre de acompañamiento de los presupuestos generales del estado para dos mil seis declaró el abastecimiento de zuia urkabustaiz

correspondiendo a la administración del estado la ejecución de las obras necesarias para garantizar el abastecimiento

el gobierno vasco a través de la agencia vasca del agua acaba de terminar la estación de depuración de aguas residuales y la red de colectores de zuia

del agua ura está implicada en la resolución de los problemas de abastecimiento y saneamiento en toda la comunidad autónoma también aquí por eso hemos terminado esta parte de saneamiento como decía con siete millónes de euros recientemente y en la parte de abastecimiento hemos facilitado todos los trámites y todos los documentos técnicos necesarios

pero al haber sido declarada de interés general del estado como usted bien sabe debe hacerlo

señora consejera que yo sepa dos mil cinco es anterior a dos mil siete en el dos mil siete cuando usted manda la carta ya estaba declarada de interés general

me quiere explicar porque yo no lo entiendo ni lo entiende nadie vale señora consejera usted con su compromiso por escrito propició que la diputación dé por válido

provocó el levantamiento de la suspensión de las normas y aprobó la propuesta municipal que era la posibilidad de construcción de quinientos diecisiete nuevas viviendas

que necesitan del abastecimiento

y hoy tenemos la autorización de quinientos diecisiete nuevas construcciones con el sistema antiguo de abastecimiento como

hoy cómo están señora consejera porque usted en el dos mil siete ya sabía

esa hoja sin anunciar que es una obra de interés general vamos a ver

de qué estamos hablando mire señora consejera usted es nombrada consejera en diciembre de dos mil doce

que los consejeros son nombrados para gobernar casi dos años de gobierno pero para usted son dos años dedicados a no gobernar se dedica a hacer oposición hace oposición al gobierno central a los ayuntamientos a diputaciones consorcios pidiendo a unos y a otros que ejecuten que inciten que hagan que presenten usted

fotos que va que viene que se reúne que me dejo de reunir eficaz

usted tiene una acumulación importante de incumplimientos obras importantísimas de gran aportación económica a los presupuestos ya veremos lo que nos trae dentro de unos días será otra vez

para los vecinos para los ciudadanos del país vasco su actitud es insufrible yo creo que en este momento y tal como ha demostrado en este año y medio su departamento es perfectamente prescindible perfectamente prescindible porque usted pone deberes a todos oiga

hacemos cuentas entre diputaciones y gobierno vasco

o los ayuntamientos o los consorcios o el gobierno central pero usted es un elemento

la realización de las infraestructuras básicas estamos hablando de infraestructuras básicas que están sin ejecutar

esto no puede ser esto no puede ser realmente creo que usted verá pero aquí hay que tomar otra dirección y alguien tiene que tomar una determinación así no se puede seguir hablamos de infraestructuras básicas de abastecimiento y saneamiento y usted como si estuviera aquí de visita oiga que no

para decirle a las diputaciones a los consorcios al gobierno central lo que tienen que hacer haga usted lo que le corresponde y lo que tiene comprometido

señora lópez de ocariz usted a mí me cae bien qué le vamos a hacer suele trabajar

en la comisión y estaba yo acostumbrada a recibir propuestas

trabajos en colaboración a concertar a colaborar a coordinar se llama así no se llama pasear no se llama ir de aquí para allá no se llama sacarse fotos se llama concertar coordinar colaborar

que tengo el honor de dirigir es un departamento que es transversal y que además tiene

o distribuidas entre los diferentes niveles de administración el territorio

en todos los niveles institucionales por tanto nos toca estar continuamente haciendo esas labores no poniendo deberes nos toca estar haciendo labores de coordinación de concertación y de colaboración

desde los concejos alaveses con los que estamos intentando hacer trabajos colaborativos para diferentes cuestiones como pueden ser por ejemplo los montes de vitoria hasta el gobierno central pasando por los municipio y pasando por las diputaciones

me reclama señora lópez de ocariz me lo reclama por ejemplo cuando estamos hablando de la elaboración

me reclama usted que dé paso a las diputaciones que colabore que concierte que coordine me pide eso y eso es lo que nosotros intentamos hacer

volviendo al caso de zuia al tema del abastecimiento pues efectivamente está ese proyecto hecho y prácticamente a la vez que el gobierno vasco en aquella época en el año dos mil cinco dos mil seis estaba elaborando ese proyecto el gobierno español declaró

una obra de interés general y cuando usted sabe cuando el gobierno español declara en este caso fue una ley de acompañamiento presupuestario declara el veintinueve de diciembre de dos mil cinco que esta es una obra de interés general del estado

lo que no quita para que nosotros desde aquí y lo hemos hecho también en otras circunstancias y lo vamos a seguir haciendo también intentemos facilitar las cosas colaborar con el gobierno español

lo antes posible terminamos el proyecto hicimos la tramitación hicimos la colaboración

con la dirección del parque del gorbea porque es un sitio muy sensible como usted bien sabe no solamente por los problemas de abastecimiento que hay sino también porque estamos en una zona naturalmente sensible y por eso también hicimos los trámites pertinentes

de cara a ver cómo era la convivencia con todas las cuestiones que hay que preservar desde el punto de vista del medio natural así los dos aspectos

y por otra parte también las necesidades de abastecimiento de los vecinos que efectivamente nos preocupaban porque

y en la época de estiaje tiene problemas de abastecimiento

por las tomas que abastecen a los municipios de la zona ahora bien también hay que decir que el tiempo ha pasado

tampoco se han cumplido en su totalidad tampoco ha crecido la población y en este momento

lo que no quita para que esas obras haya que hacerlas nosotros seguimos insistiendo ante el gobierno español le pido que me ayude

si las declaró de interés general será porque pensaba hacerlas bueno nosotros hemos facilitado los documentos técnicos los proyectos están listos está hecha toda la coordinación

con los entes forales locales parque del gorbea está todo hecho

cuando quiera me acompaña y lo solicitamos eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea